así mismo se incluirán en el estado de ingreso de los presupuestos los recursos

que conformarán el remanente de dicho ejercicio el remanente de cada ejercicio se obtendrá de sumar el remanente del ejercicio anterior los ingresos efectivamente recaudados en el ejercicio en curso

hau da beraz joko esparrua hauek dira joko arauak esta proposición no de ley encuentra

en el tratamiento recibido por los centros públicos para sus gastos de funcionamiento y mantenimiento para dos mil trece ahí encuentra su origen porque para el cálculo de sus gastos se tuvieron en cuenta los remanentes de gestión de cada centro de tal manera que el que mejor gestión

el más ahorrador o el que coyunturalmente y en la confianza de que todo funcionaría como durante los últimos quince años desde mil novecientos noventa y ocho había por ejemplo dejado la carga de fuel para enero fue sorprendido en su práctica

por la atribución de gastos de funcionamiento hecho a los centros una atribución que desde nuestro punto de vista vulnera claramente la autonomía de gestión económico financiera que se venía ejerciendo y aplicando durante los quince años y que desde luego costó muchísimo implantar

como les digo señorías durante quince años se han mantenido era una verdadera necesidad de los centros educativos el establecer

eran las reglas de juego entre administración y centros educativos reglas

con esta decisión del departamento una decisión desde nuestro punto de vista

sorprendió a los centros y los dejó a los que más tenían o a los que

un gasto más importante absolutamente

supuso evitar la locura que se producía todos los años en diciembre una fecha que

como ustedes saben señorías termina en junio la locura

de los centros de tener que cuadrar a cero el capítulo de gastos de funcionamiento pues cualquier remanente desaparecía aunque pudiera ser necesario para poder pagar una factura que fuera llegar en enero esto ocurría

hemos conocido a centros educativos que para comprar un ordenador utilizaban las facturas de la lejía hemos conocido

falsas con el librero de la esquina aprovechando la amistad hemos conocido centros que tenía centros educativos que se veían forzados a tener cuentas

economía sumergida esto realmente se paró en seco en el momento que entró en vigor el decreto de mil novecientos noventa y ocho que permitía que ahormaran los remanentes y que los mantuvieran y que pudieran hacer una gestión

muchísimo más rigurosa muchísimo más eficiente y más ahorradora

costumbres y prácticas de los centros educativos de tener que gastar

aunque no fuera necesario en diciembre por lo tanto supuso dotar a los centros de la capacidad de planificar

que no fuera a ser costeado por la dotación económica correspondiente a un solo ejercicio si no es a riesgo de dejar desatendidas las partidas destinadas a funcionamiento diario supuso en definitiva dar tranquilidad a los centros en su gestión permitirles competir permitírselo

y reconocer la madurez de los centros para gestionar sus gastos e ingresos a corto pero también a medio plazo supuso sin duda la apuesta de largo de la autonomía económico financiera de la que avalaba la ley de la escuela pública del año noventa y tres

esto es lo que vino a mal parar con la entrega de los gastos de funcionamiento a los centros en el año dos mil trece una decisión que desde luego

porque hemos de aprovechar esta proposición no de ley para parar en seco esta práctica ejercitada solo durante el año dos mil trece porque es una práctica

es una práctica que vulnera la gestión económico financiera que les permite ahorrar y ser rigurosos y es una práctica

y en los usos y costumbres de los últimos quince años

porque lo que hemos hecho ha sido vulnerar la confianza de las direcciones de los centros

por lo tanto voy apresurarme en gastar y estamos en noviembre por eso el debate de esta proposición no de ley tiene todo el sentido a pesar de

y estar debatiéndola en noviembre sé

a los centros posterior a todo el clamor popular que se suscitó en los centros educativos después de la primera atribución sé que ha habido otros libramientos pero es muy importante pensar que realmente esto se hizo mal y no se puede volver a repetir

si decide esto lo que tenía que haber hecho es un recálculo un recálculo del módulo que corresponde a cada uno de los centros educativos es decir seguir

de que cada centro educativo público y estamos hablando de los públicos señorías que no estamos hablando de los concertados

ustedes mantienen en el módulo de concierto exactamente igual la partida de gastos de funcionamiento en el doce en el trece

por tanto está igual mantenida sin embargo a los públicos oiga el trece les hicieron verdaderamente

de que efectivamente esto ha sido un año en el que no se ha gestionado bien pero que se va

el uso la costumbre la ley la normativa de que efectivamente van a tener

ese es el ahorro y si uno tiene menos recursos

porque ha habido centros que efectivamente la factura de la caldera les venía en enero y no la han podido pagar

de agua que han crecido y se han visto en esta operación por tanto señorías esta proposición no de ley para corregir el rumbo para dar un mensaje de confianza a las direcciones de los centros educativos que la están esperando y para decir que efectivamente puede que haya menos recursos y si hay menos recursos en el presupuesto dos mil catorce que habrá

pero algo menos que en el doce si lo hay desde luego

será como en los últimos quince años en función del módulo de cada centro y no desde luego en función de sus remanentes por cierto ahora no tendrán ninguno pero

de llevárselo a los centros educativos para que se restaure la confianza y para que efectivamente hagan una gestión mucho más rigurosa que la otra fórmula aporta porque la otra fórmula la de quitar los remanentes lo único que aporta es derroche

partíamos de la iniciativa original nosotros presentamos una enmienda de totalidad que pretendía

introducíamos de hecho el rechazo a los recortes sociales especialmente en lo que se refiere a la educación pública esto se ha introducido en esta transaccional y por lo tanto

creo sinceramente que los argumentos expuestos por la señora celaá son

son argumentos muy contundentes y por lo tanto lo que esperamos es que si esta transaccional finalmente se vota y se aprueba el gobierno tal como se ha dicho corrija lo que ha hecho durante el ejercicio dos mil trece y tome en consideración y apunte lo que este parlamento supuestamente le puede exigir en los próximos minutos ya digo creo que es un tema muy claro la señora celaá ha expuesto los argumentos de una manera muy clara y muy contundente en todo caso esperamos también los argumentos

expondrá para defender su enmienda de totalidad en todo caso nosotros votaremos a favor

estamos también de acuerdo con la exposición del grupo proponente hemos firmado por eso una enmienda de transacción con el grupo socialista y con el grupo

es verdad que yo creo que tenemos la oportunidad de analizar este asunto

y yo creo que lo más importante es fijarnos en que la financiación y la autonomía de los centros viene reflejada

donde se hace referencia expresa de la autonomía de gestión de los centros

en los artículos cincuenta y cuatro y cincuenta y cinco en la autonomía económica financiera

artículos cincuenta y seis cincuenta y siete y cincuenta y ocho que hacen referencia a la misma

que dice y yo creo que sí que merece la pena que lo leamos

del presupuesto del centro se seguirá el siguiente procedimiento cada año a requerimiento de la administración educativa

o en su caso de la comisión permanente elaborará la relación detallada de las necesidades económicas del centro en lo que se refiere a los gastos que deben integrarse en su presupuesto propio los centros

con el visto bueno del órgano máximo de representación se haga llegar al departamento de educación etcétera la relación de necesidades se ajustará a la estructura presupuestaria previamente definida

habla ya de que será el departamento de educación

no solo la situación objetiva del centro sino también su posición relativa en relación a otros centros de la red pública para compensar en lo posible las desigualdades de origen existente antes la población escolar etcétera bien habla

y creemos perfectamente que se define aquí ya una atención singularizada de caso por caso a la hora de hablar

de los centros educativos es verdad como relataba la proponente que el gobierno al anunciar que incorpora los remanentes de gestión de dos mil doce para hacer la atribución

lo que podemos prever es que

que la eficiencia buscada por los centros educativos en la gestión del gasto

quede anulada porque efectivamente como ha dicho la señora celaá puede ser que el más ahorrador resulte castigado

aduce que puede también que los remanentes

nos hablen de que ese centro no necesita ese volumen de recursos

una injusticia castigando a quien mejor ha gestionado al parecer las direcciones de los centros públicos recibieron cartas

comunicándoles que para elaborar el capítulo gastos y funcionamiento y mantenimiento sí van a tener en cuenta ya esos remanentes lo que provocó pues cierta

en determinados centros educativos donde ese capítulo de remanentes era significativo nosotros por eso nos hemos sumado a que el entendiendo que el gobierno va a tratar de buscar una solución

y desde luego apelando y apelamos al diálogo del departamento con los centros sí que es verdad que a priori creemos que esa medida

hay riesgo de que cale ese mensaje de que si no lo has gastado

se busquen las fórmulas muchos centros para tratar

gastar como sea y de cualquier manera los recursos propios antes

sea necesario o no y yo creo que eso es algo que nos debe preocupar

en los centros con objeto de que el departamento no retire esos remanentes y aprovechar de alguna manera esa capacidad de gasto para comprar cosas innecesarias

eso nos preocupa nos preocupa que haya quien pueda tener

se penalice a quien ha gestionado mejor a quien mantiene dinero en sus cuentas

eso qué nos lleva a pensar o qué les lleva a pensar a muchos

o te gastas el dinero o el gobierno se lo lleva

a quien está gastando y no ahorra nada de lo previsto en sus presupuestos anuales bien yo creo que eso hay quien advirtió que puede provocar

quien dijo que se venía haciéndolo algunos años que incluso

pagaban facturas no realizadas con objeto de presentar balances que cuadrasen esos remanentes nosotros

que en este momento el gobierno tiene que velar

por una ejecución rigurosa de los presupuestos creemos que se tiene que exigir a los centros una gestión deficiente de los recursos públicos está claro

cuál tiene que ser la redistribución de esos remanentes allí donde considere que efectivamente puede permitir una gestión diferente de esos presupuestos para el próximo año

manteniendo un diálogo de manera singularizada con cada uno de los centros y en todo caso nosotros creemos que a día de hoy y puesto que se deben encontrar las fórmulas adecuadas antes de tomar esa decisión hemos creído oportuna

no de ley del grupo socialista se dice que el departamento de educación política lingüística y cultura retirará la propuesta de presupuesto individualizado

y mantenimiento de los centros públicos para el ejercicio dos mil trece por ser contrario a dicha autonomía

hablaremos luego pero es una afirmación incierta en la enmienda de transacción

dice el parlamento vasco insta al gobierno vasco a seguir calculando como hasta diciembre de dos mil doce los gastos de funcionamiento de los centros en función del módulo correspondiente

ahorro o por otras circunstancias puedan disponer los centros educativos explicaremos también esto asimismo el parlamento vasco rechaza los recortes en gastos de funcionamiento

por considerar la educación pública un servicio esencial para comenzar diré que estamos de acuerdo y defendemos la autonomía de los centros la propuesta

y es que se han producido recortes cuando sabe perfectamente que no ha sido así y que todos los centros han recibido los recursos necesarios para sus gastos de funcionamiento

en cuanto al cálculo de los gastos se hace igual que siempre pero buscando un tratamiento presupuestario y contable adecuado

quiere quedar como la fiel guardián para que no haya recortes a sabiendas de que no los ha habido

en la facultad de gestionar su actividad económico financiera que se concreta

de su proyecto de gestión cuya realización anual se plasma en el programa anual de gestión contendrá todos los gastos tanto de funcionamiento ordinario como de inversiones que se preveían incurrir así como los ingresos que se prevean obtener para atender dichos gastos

a treinta y uno de diciembre de dos mil doce el remanente total de los centros de infantil primaria y secundaria ascendía a un total aproximado de cuarenta millónes

superior al gasto de funcionamiento previsto para el año dos mil trece

creo que estaremos todos de acuerdo y así lo ha dicho también el señor oyarzabal que en la época que estamos atravesando la gestión de los recursos debe hacerse del modo más eficiente posible pues bien veamos lo que dice la normativa vigente el artículo cincuenta y cuatro

de autonomía de gestión de los centros dice que además de los recursos en su punto dos además de los recursos a los que se refiere el apartado anterior donde explica cuáles son podrán otorgarse a los centros dotaciones complementarias con cargo al fondo de compensación que se regula en el artículo diez asimismo la administración educativa

a los centros que en razón de los proyectos educativos y planes anuales de los centros que así lo requieran con cargo a las partidas que se consignen a estos efectos en los presupuestos esto es lo que se ha hecho este año se pretende hacer en el futuro

dice que cada centro aprobará un proyecto de gestión el suyo propio individualizado el artículo cincuenta y ocho dice

y su modelo de gestión contable integral y de tesorería el artículo cincuenta y nueve lo ha leído el señor oyarzabal en donde se vuelve a recalcar la

el artículo sesenta dice los centros en los términos que se determinen reglamentariamente podrán incluir entre los ingresos de su presupuesto los recursos que resulten excedentes y destinarlos a los gastos que estos dispongan comunicando dicha decisión al departamento de educación

a la administración sobre la gestión económica del centro reglamentariamente se determinará el modelo de las cuentas de gestión que deberán rendirse a estos efectos así como la periodicidad con que ello se lleva a efecto y efectivamente se ha regulado reglamentariamente

el reglamento en vigor nos dice en el artículo primero la estructura del estado de ingresos del presupuesto del centro será la siguiente uno remanente del ejercicio

remanente del ejercicio anterior señora celaá el artículo séptimo dice al comienzo de cada ejercicio presupuestario cada centro remitirá a la delegación territorial de educación el presupuesto inicial debidamente cumplimentado y aprobado por el órgano máximo de representación

los centros elaborarán las cuentas de gestión una vez aprobadas por el órgano máximo de representación se remitirán a la correspondiente delegación territorial de educación

con estas premisas comprenderán que no podemos suscribir los puntos dos y tres de la transacción propuesta por el grupo socialista

contra la normativa vigente y en el segundo caso porque los recortes no se han producido lo que sí se ha visto ha sido que había un tratamiento presupuestario

que no era idóneo de los remanentes y por lo que se está resolviendo esta cuestión con los propios centros

que se hayan realizado dos aportaciones posteriores al presupuesto

por lo tanto recortes cero por todo ello nosotros hemos ofrecido la siguiente propuesta de transacción legebiltzarrak ondorengoa eskatzen dio

mucho éxito esta propuesta pero bueno lo que insisto para terminar es que seguimos diciendo y además así lo hemos hecho y lo estamos demostrando que defendemos la autonomía de los centros y que para ello buscamos

el mejor modo de hacerlo por cierto como todo el mundo conoce esto es lo que ya está haciendo el gobierno de acuerdo con los centros de acuerdo con los centros

para estudiar el tema del tratamiento idóneo de los remanentes

por lo tanto ese miedo que manifestaban a que pudieran querer gastar por miedo a que se les quitase y tal absolutamente descartado porque es el gobierno con los propios centros el que va a establecer el tratamiento de los recursos

seguir calculando como hasta diciembre de dos mil doce los gastos de funcionamiento de los centros en función del módulo correspondiente dejando fuera del cálculo remanentes de gestión de los que por ahorro o por otras circunstancias puedan disponer los centros educativos gure ikuspuntutik hau da kakoa

sí agradezco al os grupos que van a apoyar esta iniciativa agradezco

su apoyo muy especialmente y además quiero decirle al señor agirrezabala que nunca

relativa a los centros en el país vasco nunca por tanto

y es así sí le diré al partido popular que los remanentes o el acopio de remanentes no indica

de que los centros tienen mucho si efectivamente quedan muchos remanentes lo que habrá que hacer es actuar sobre el módulo

qué pasa con el módulo es que están recibiendo mucho pero ciertamente los remanentes proceden precisamente de sus excedentes

muchas veces se hacen precisamente para acometer algo que cuesta mucho más un equipamiento en los centros de formación profesional o cualquier otra operación que no han podido acometer con los gastos habituales que con el capítulo de gastos que aporta el departamento de educación

de manera muy particular también y desde luego al señor arieta araunabeña le tengo que decir que ha venido usted aquí a hacer un papelón

porque usted ha querido tratar de cubrir enmascarar con una filosofía

lo que ha sido una pésima gestión del departamento de educación en este capítulo porque dígame si efectivamente en la ley o en la normativa está tan claro es así como usted dice que no lo dice porque usted no nos ha leído ni un solo extracto que afirme

los remanentes han de ser puestos en la bolsa general para ser devueltos de ninguna de las maneras los remanentes en el decreto que es precisamente

esto reglamentariamente de acuerdo la ley dice lo que dice y desde luego los que estuvimos en su fabricación si me permite sabemos lo que quiere decir la ley

y sino dígame usted si ustedes han estado haciéndolo todo mal porque nosotros tenemos

con respecto al reglamento y durante quince años esta comunidad ha respetado los remanentes qué ocurre que todos los centros educativos ahora tienen unos extensísimos remanentes oiga pues entonces habrá que mirar el módulo porque

por qué ustedes ahora presentan una proposición no de ley en la que dicen que

con los centros educativos para acordar el mejor tratamiento si lo dice la ley para qué acuerdan están acordando están tratando de acordar porque ustedes metieron la pata en el ejercicio dos mil trece por eso se han acercado ahora a los centros que por cierto protestaron casi todos en sus memorias luego recortes aquí pues no sé díganos

porque objetivamente y esto es una cosa verificable los datos de los gastos de funcionamiento de los centros desde el dos mil trece

y la propuesta del dos mil catorce aún incluyendo alguna cantidad mayor

por lo visto pero el único que no ha apreciado los recortes son ustedes son ustedes porque por cifras

ahora resulta que van a acordar están en diálogo con los centros haber hecho ustedes este ejercicio en el dos mil trece y haber mantenido la costumbre de respetar los excedentes de los centros pero no lo hicieron entonces lo están haciendo ahora

ustedes corrigiendo sus propios pasos

señal de que se han equivocado en la práctica señal de que se han equivocado

el reglamento que lo conocemos porque hemos trabajado con él permanentemente

obtenidos de los centros y efectivamente en el capítulo de ingresos están los remanentes

como diferenciados de los ingresos recibidos del departamento de educación

esos remanentes son tenidos en cuenta a la hora de la liquidación de los presupuestos generales

no para ahora usted mire me devuelva los remanentes no si ustedes consideran que los gastos de funcionamiento de los centros son muy altos

que también se puede ser equitativo incluso repartiendo con equidad con justicia con igualdad y con proporción cuando hay recursos escasos

y ese ejercicio es el que han empezado a hacer ahora pero no en el dos mil trece su propia propuesta

araunabeña nos dice que efectivamente ustedes están corrigiendo

confirmar nuestro apoyo a esta enmienda que hemos firmado a pesar de los prejuicios

vamos a mantener nuestro apoyo a la autonomía de los centros como siempre hemos hecho en esta cámara y desde luego también a defender una

una gestión eficaz de los recursos públicos y desde luego también una atención en este caso como lo hacemos a través de esta enmienda de transacción una atención específica

que en este momento necesitan una atención singular

los remanentes han de ser devueltos dice la señora celaá eso lo dice usted

el gobierno lo que ha dicho en todo momento es que el presupuesto se debe de gestionar del modo más eficiente

es que si la norma establece con esa claridad por qué ustedes dicen que hay que llegar a acuerdos por que claro las normas establecen unas obligaciones que luego hay que implementarlas señora celaá

pues se va aprendiendo se va haciendo por lo tanto pues no me diga que eso lo hace todo el mundo y todo el mundo aprende y todo el mundo evoluciona y unas veces hacen unos las gestión de una forma y otras veces se mejora

mire señora celaá si usted realmente creyese lo que dice

situaciones tan graves no hubiera traído esta proposición el catorce de noviembre

y el presupuesto de gastos en proceso de cierre por que es su grupo el que da la prioridad a las proposiciones que

mayo junio o julio o en cualquier caso cuando ha conocido los datos de gestión de los centros o es que claro esos datos desmentían lo que está usted diciendo claro

y que lo está haciendo con los propios centros mediante dos comisiones creadas al efecto mejorando la gestión señora celaá implementando mejor la norma señora celaá ha querido justificar

los centros quieran volver a hacer trampas ha dicho oiga mire

sí ha dicho ha dicho entonces no me diga eso porque ya le digo que está el gobierno tratando está tratando con los centros en dos comisiones precisamente la forma de gestionar por lo tanto

no tiene agarre hombre me dice que yo he hecho un papelón me parece normal que usted quiera convertirse en el referente

lo que pasa que yo le pido que lo haga con el rigor debido que es lo mínimo exigible a quien ha detentado una responsabilidad como la suya

la forma de gestionar por los intentos de mejora en la gestión pero estos intentos no los tome usted como un ataque al que usted gestionó mal señora celaá que todo el mundo aprendemos todo el mundo tratamos de mejorar porque si no

mire para terminar señora celaá le voy a decir que si usted realmente hubiera querido evitar los supuestos atropellos que dice qué mejor que apoyar la búsqueda del acuerdo para evitar

en las anteriores formas de gestionar porque no se cambia ni el cálculo

se trata de buscar una mejor gestión de los mismos una gestiónidónea que no tenga que no haya cantidades que puedan ser utilizadas en un momento determinado y que en una situación de crisis como he dado antes el dato supera de largo de larguísimo incluso todo el presupuesto necesario anual entonces eso hay que buscar la forma más eficiente de hacerlo y eso es todo lo que está haciendo este gobierno y nada más señora celaá muchas gracias

el parlamento insta al departamento a que entendiendo que la menor aportación de dicho

usted está diciendo que a los centros la aportación que va a llegar va a ser

el gobierno vasco junto con el gobierno de la rioja iniciaron hace algún tiempo los trámites para incluir en la lista de bienes culturales

la candidatura del proyecto denominado como el paisaje cultural del vino y el viñedo de la rioja y rioja alavesa esta candidatura
ha sido incluida isiltasuna mesedez isiltasuna mesedez

ha sido incluida en la lista de candidatos a patrimonio de la humanidad ha iniciado su

desde el grupo popular consideramos esta candidatura como una iniciativa importantísima para rioja alavesa y consideramos que para que esta candidatura tenga éxito

los agentes sociales económicos culturales de manera que la sociedad alavesa se sienta identificada con este proyecto la cultura de la viña y el vino configura y caracteriza el paisaje y la vida de los habitantes de rioja alavesa el cultivo de la vid y la elaboración del vino son los que han forjado desde antiguo la relación del hombre con esta tierra esa interrelación

el vino de rioja desde antiguo la elaboración del vino ha representado mucho más que una actividad económica

ha generado un patrimonio costumbres y tradiciones

el paisaje de rioja alavesa lo conforman la actividad productiva de la vid caracterizada por la composición de su tierra

la sierra de cantabria que protege este territorio de los vientos y lluvias del norte el río ebro que une y da riqueza a estas tierras y

lo que hace de esta actividad el elemento principal para el desarrollo de la vida de sus habitantes consiguiendo alcanzar un aprovechamiento racional de los recursos naturales las terrazas que se ven en el paisaje de rioja alavesa es otro de los elementos que más llama la atención a quien visita esta tierra el viñedo desde muy antiguo se disponían las zonas menos productivas y más áridas que no eran aptas para la producción de cereal

de manera que generaba un espacio adecuado para plantar la viña muchas de ellas se mantienen y otras se han recuperado lo que da a ese paisaje singular

es un monocultivo salvo excepciones puntuales en rioja alavesa también es fácil observar las primeras construcciones relacionadas con el vino

y las modernas estructuras diseñadas algunas de ellas por los más prestigiosos arquitectos mundiales también podemos observar sus pueblos su excepcional

muchos de ellos conjunto monumental y por si faltaba algo el camino de santiago cruza este valle camino de cultura y comercio que también ha aportado una forma de ser y hacer a sus habitantes glosar las bondades del paisaje de la rioja de la viña y el vino de la rioja alavesa es muy fácil salen a borbotones lo mejor es visitarla

el valor y el peso determinante de esta candidatura lo lleva sin ninguna duda rioja alavesa lo importante es conseguir que la candidatura

del vino y la viña de rioja y rioja alavesa prospere porque esto significara un espaldarazo importante para la proyección de rioja alavesa y de álava en el mundo

traducirse en promoción del turismo etnológico y de naturaleza difusión de la cultura del vino y desarrollo de actividades económicas complementarias

como decía el gobierno vasco y el gobierno de rioja han iniciado los trámites para conseguir esta calificación y desde el grupo popular entendemos

la participación de la diputación foral de álava que desde sus competencias en producción agrícola en medio ambiente en infraestructuras en entidades locales

además se han olvidado de los habitantes de rioja alavesa de sus ayuntamientos de la cuadrilla de los concejos como administraciones locales de los diferentes agentes sociales

y culturales que deben ser conocedores del proyecto de lo que les puede aportar y también de las obligaciones que este reconocimiento les puede suponer

de nuestra iniciativa es esta llamada de atención sobre la forma de gestión de esta candidatura y sobre la necesidad de trabajar codo con codo entre las instituciones y también con los habitantes de rioja alavesa no nos olvidemos del objetivo conseguir que la candidatura de paisaje cultural del vino

y para ello es imprescindible contar con el apoyo de todas las administraciones competentes y con los habitantes de rioja alavesa

enmiendas que aportan más

aspectos que hay que incidir en la tramitación de esta candidatura y hemos llegado a la enmienda de transacción que todos ustedes tienen

en la preparación de la candidatura del paisaje cultural del vino y el viñedo de la rioja y rioja alavesa que elabore en coordinación con la diputación foral de álava y tras

alavesa un informe que sea refrendado por los mismos

derivadas de dicha declaración instamos también al gobierno vasco a que impulse junto con la diputación foral de álava

un plan de actuaciones en materia de turismo cultura ocio naturaleza medioambiente infraestructuras desarrollo económico y social que ayude a conseguir la calificación que se busca

y las mejores condiciones de vida de sus habitantes esta es la enmienda que ponemos a votación

existe ya en esta cámara antes de entrar al debate sobre el asunto que nos atañe un amplio consenso sobre los términos en los que esta iniciativa debe entrar a trabajarse desde las instituciones

a los que fueron aprobados en las juntas generales de araba y que han motivado que hoy debatamos sobre esto mismo euskal herria bilduk mahai gainean jarri nahi ditu zenbait irizpide

la primera de las consideraciones es la necesidad de que este largo proceso ya que se trata de una tramitación que durará en el tiempo

ver finalizada debe ser bajo parámetros participativos debemos involucrar a la población de rioja alavesa no solamente de una manera pasiva sino que debemos hacer que este proceso sea participativo desde el inicio que sean las propias gentes de la rioja alavesa

y principios de lo que es el objeto de la declaración hay que recordar que la unesco está priorizando aquellos proyectos que parten de la base de la ciudadanía de ahí que estemos poniendo encima de la mesa que sea la propia gente de la rioja alavesa

los objetivos para las próximas décadas esto será valorado por la unesco tal y como lo está haciendo ya en el presente para ello todos seguramente tanto nosotros y nosotras que estamos en esta cámara como la ciudadanía de la rioja alavesa los agentes sociales y económicos y las instituciones locales debamos conocer mejor qué supone

patrimonio cultural y natural de la unesco qué obligaciones supone y qué consecuencias puede tener en la actividad económica en el desarrollo rural en el desarrollo cultural

qué puede hacer cambiar de las vidas de los y las ciudadanas de la rioja alavesa

berretsi egingo dutela por otra parte nos gustaría hacer mención a que esta candidatura se presenta conjuntamente con rioja españa pero no se ha tenido en cuenta que rioja alavesa comparte también espacio en lo paisajístico cultural

y una vez más se ha obviado este hecho y los motivos políticos vuelven a primar penagarria benetan saiatu ez izana alor honetan nafarroarekin batera zerbait egitea herri gisako ikuspuntua emateko una pena no ser capaces incluso en este asunto de intentar hacer algo

iniciativa un perfil nacional saliéndonos de lo que desde el estado español se hace llamar marca españa y apostando así por buscar ámbitos de encuentro con nafarroa

debería poder ser nombrado patrimonio cultural y natural de la unesco y gestionado por lo menos como si así lo fuese por su historia cultura yacimientos arqueológicos monumentos megalíticos paisaje vivo y evolutivo cultura

esto supondría que todo el territorio debería ser protegido y que se deberían impulsar desde las instituciones planes concretos de desarrollo y defensa de nuestro herrialde de su entorno ecológico como marco en el que se desarrollan las actividades humanas

nuestros pueblos de pozos de gas contaminar nuestros ríos ni tampoco

natural y de vida así podríamos parar la intención que mantienen todos ustedes de poner en marcha la extracción de gas esquisto así podríamos detener

ez bakarrik prozesuaren bukaeran baizik eta prozesuaren hasieratik gaurtik bertatik por otro lado hemos querido poner encima de la mesa la falta de nafarroa en este proyecto y sin embargo que se haya contado con rioja españa sin ningún tipo de problema para lanzar la candidatura

para la cultura y para el día a día de la ciudadanía datos que desconocemos todos a día de hoy también en esta cámara

los alimentos y acabarán con la actividad económica de cientos alaveses y alavesas con el patrimonio cultural y con su historia

para finalizar me gustaría denunciar también la hipocresía del partido popular en esta cámara una iniciativa que proviene de juntas y consensuada por todos los grupos allí presentes

no puede ser consensuada y firmada por todos aquí por culpa del partido popular ustedes donde gobiernan en araba en sus instituciones son capaces de llegar a acuerdos con eh bildu y firmarlos en esta cámara no son capaces

el grupo popular compite aquí con el grupo mixto en la demostración pública de un mayor inmovilismo demagogia barata y ultranacionalismo español ustedes sabrán ustedes representan ese politiqueo falso de salón que avergüenza a la ciudadanía y que les aleja de la misma

en favor y para la ciudadanía aquí y en todas las instituciones pero también fuera de ellas

a pesar de ustedes de eso estén seguros besterik ez eskerrik asko

presidenta señorías el grupo socialista como ya se ha reflejado en la enmienda transaccional que se ha repartido está

su posición y su decisión política a esta candidatura de la rioja junto la comunidad autónoma de la rioja a patrimonio de la humanidad

es así entre otras razones porque nos sentimos muy concernidos en dicha iniciativa

socialista en el año dos mil doce cuando se firmó el acuerdo entre el gobierno de la rioja y el gobierno vasco para impulsar

comunidad como candidata

nosotros estamos de acuerdo con que se solicite como se planteaba en el origen de la iniciativa que tiene que haber una coordinación institucional y que tiene que ser con la diputación foral de álava también estamos de acuerdo con que tiene que haber un informe

qué significa este tipo de opciones y qué resultados puede tener en el caso de obtener de conseguir que sea declarado patrimonio de la humanidad también estamos de acuerdo con que hay que impulsar aquellos aspectos lógicos y razonables

del espacio en el que estamos hablando y que en la iniciativa

ya se reflejaban como el turismo la cultura el ocio o el medioambiente pero también considerábamos que esto había que ampliarlo por eso de las enmiendas que se han presentado especialmente de la enmienda que presentó el grupo parlamentario socialista donde se ha ido trabajando en un consenso

algunas cosas más y donde además de decir que tiene que haber una atención sobre el desarrollo económico de la

tiene que haber también una política en relación con las infraestructuras y

esto se pueda desarrollar que contar no solo con la diputación foral de álava sino con otras instituciones

y sociales que también tienen mucho qué decir desde la perspectiva de la rioja alavesa que es la que nosotros nos compete porque será

comunidad autónoma como decidan cómo lo quieren llevar bien por qué hemos hecho esta enmienda

una transaccional y por qué este es un momento para hablar no solo

patrimonio de la humanidad sino también de algunas cosas más pues por que en la rioja alavesa hoy hay problemas en sus comunicaciones

en la rioja alavesa hoy hay problemas con el suministro de agua de boca hay problemas con la depuración de aguas hay problemas

el acondicionamiento de ríos y de arroyos hay problemas en la reparación y mantenimiento de caminos agrícolas en la implantación de las energías renovables en el suministro del gas como hemos visto también en esta cámara

vasca de la competencia que se posicione sobre el suministro de gas a la bastida pero que también afecta a los demás pueblos en

y necesidades en la mejora de la red eléctrica en la cobertura de la telefonía móvil en servicios sanitarios en que los convenios con la comunidad y funcionen bien sin tensiones hay problemas en la recuperación de espacios degradados se necesita un precio digno para la uva hace falta un apoyo comercial a los pequeños productores para que puedan salir al mundo hace falta que se trabaje más en la recogida

de residuos en la rioja es necesario trabajar en una implementación de sus actividades con

que es la del comercio es decir son problemas que afectan directamente

afecta a los alaveses y alavesas afecta a la situación económica y social pero también afecta al que

por el reclamo de lo importante que es la rioja alavesa desde el punto de vista patrimonial paisajístico económico de cultura de ocio y por lo tanto si queremos que una candidatura no solamente por sus bondades naturales pueda tener un éxito y pueda ser merecedora de ese reconocimiento como patrimonio de la humanidad sino que además de a sus habitantes

una calidad de vida es necesario que hablemos también de este tipo de cosas y por eso nosotros hemos planteado una enmienda que después

se ha juntado con la iniciativa y con otros grupos para poder hacer esta enmienda transaccional donde queremos decir

que hemos aportado y que se ha incorporado que queremos hablar también de este tipo de problemas y que las instituciones no debieran de quedarse solamente

como aspirante a ser declarada patrimonio de la humanidad sino que también debieran de aprovechar esa circunstancia para ahora que nos damos todavía más a conocer de lo que ya somos conocidos y que queremos cautivar conquistar y seducir

es el momento también de ponerla a punto de mejorar muchas de estas cosas

y que podrían reforzar considerablemente la calidad de vida de los habitantes

de los visitantes cuando lo hagan ocasionalmente y la potencialidad de su actividad económica que no solamente es beneficiosa para la rioja alavesa que también lo es para álava y que también lo es para el país vasco

diré una última cuestión que venía reflejada en nuestra enmienda que presentamos en la que pedíamos

nominal de los municipios de los pueblos afectados

aspiración a declaración de patrimonio de la humanidad tanto de la rioja comunidad autónoma como de rioja alavesa

tampoco era necesario porque en realidad este es un aspecto que se trata de una información

ya la pedimos porque hay un detalle que no sé si habrá pasada desapercibido pero si se ve un poco cuáles son la relación de zonas de lugares en el mundo

patrimonio de la humanidad si se ven esas mismas referencias en el entorno europeo uno podrá apreciar con facilidad que a tenor de las informaciones que hay hasta hoy sobre la mesa

y algunas declaraciones que se han hecho pero que digamos para entendernos no están certificadas el espacio sobre el que se quiere hacer esta declaración

es un espacio de una extensión que no tiene

que pueda estar a trescientos cuatrocientos quinientos

de diámetro con nuestra comunidad y

en política hay veces donde

y es bueno separar la propaganda de la información y por lo tanto yo quisiera saber si realmente la comunidad autónoma de la rioja está hablando

los que tiene si está hablando de ciento dos que son los que podrían tener más relación directa con lo que es la rioja en el sentido del viñedo o si hay pueblos de primera y pueblos de segunda

el mismo peso dentro de esa actividad económica ni tampoco tienen el mismo peso en el paisaje y lo mismo quisiera saber en relación con la rioja alavesa nosotros en la denominación

en los pueblos que afecta a ella está clarísimo cuando nosotros hablamos sabemos exactamente de qué municipios estamos hablando pero como esta es una candidatura unitaria conjunta

se habla exactamente de lo mismo por lo tanto vamos a solicitar por escrito que se nos dé una relación nominal de todos los pueblos que están afectados

porque me consta que esto ha sido solicitado en el parlamento de la rioja y por lo menos que lo sepa yo

sailburua legebiltzarkideok eguerdi on la nonata ley del paisaje del país vasco definía en su artículo dos

cuyo carácter es el resultado de la acción e interacción de factores naturales y humanos no se trata de recomenzar a enmendar una ley que ni nació ni se encuentra en el calendario legislativo pero para comenzar a aclarar las cosas

la definición introduce un error de libro se trata de la expresión tal como la percibe la población las poblaciones no perciben los paisajes

cada uno de nosotros cada uno de los pobladores vemos cada paisaje de un modo diferente y seguramente

de la estación o del dolor de muelas o no que tengamos ya lo dijo amiel cualquier paisaje es un estado del espíritu

y como cada uno aunque lo miremos igual lo vemos diferente

para objetivar unas cualidades que determinan la calidad de un paisaje nos lo trasladan y entonces si la población lo percibe de una manera más o menos cohesionada

determinamos colectivamente si el paisaje merece la pena o debemos rechazarlo paisaia kontzeptuak hainbat erabilera ditu diziplinaren arabera

estricto sería un paisaje natural entendiendo al ser humano como una especie animal más de la biodiversidad

que nos lleva una y otra vez a mirar la biosfera como si no perteneciéramos a ella sino que

nos lleva a estas cosas pero en cualquier caso este es un tema académico menor a día de hoy paisai hau berezia da bai bere nekazal orografiagatik

bereziki arabako errioxakoek muino txikitan banatuta si a esos valores les añadimos

mostrando la continua y activa presencia del ser humano en el moldeo del territorio tenemos elementos que tras ser bien explicados por los técnicos expertos correspondientes

de que están ante un paisaje complejo de valor extraordinario y merecedor de ser protegido y ser patrimonio mundial de la unesco todo eso

ese paisaje le pueda sugerir muchos entendemos que es un paisaje que nos gusta

realmente lo percibimos como mucho más valioso diríamos que es la poesía la sensibilidad y la técnica trabajando juntos

egin nahi duela desde nuestro humilde punto de vista subjetivo rioja alavesa presenta un paisaje mucho más singular y atractivo que rioja alta pero no vamos a molestar y además entendemos que la colaboración con los vecinos puede dotar de fuerza y cooperación a un proyecto que en ningún momento se ha querido sea exclusivista

este lunes pasado el comité español correspondiente ha aprobado la candidatura de paisaje cultural de rioja alavesa

digamos que el primer paso de la larga carrera ya está dado hori esanda eta pauso hori ospatuz euzko abertzaleak taldearen ustez lehentasunezkoa

la posible declaración de patrimonio mundial y de paisaje cultural protegido deberán ser elementos determinantes para su avance en un desarrollo turístico y económico

y sostenible no obstante aspectos como evitar explanaciones de gran superficie un cuidado exquisito de las nuevas infraestructuras

armónico serán también elementos que habrá que observar en el futuro aunque no parecen difíciles de lograr en tanto llevan miles de años cuidando una serie de aspectos materiales e inmateriales que les permiten aspirar a una calificación de carácter mundial

y no requieren de mayor debate pero el consenso de los pobladores se nos revela fundamental entre otras cosas porque la protección de un territorio de treinta y uno mil seiscientos hectáreas en rioja alavesa

especialmente para las locales de rioja alavesa si bien desde una perspectiva de atracción los mayores beneficiarios del paso a dar son los propios riojano alaveses

de un paisaje que gracias al esfuerzo de su mantenimiento y protección podrá mantenerse en el futuro tan espectacular de ahí que entendamos que aunque a todos nos gustaría su calificación por unesco deben ser las

asuman se responsabilicen y nos lo ofrezcan al resto de vascas y vascos

nuestro apoyo al proyecto a la colaboración interinstitucional y sobre todo a las gentes de rioja alavesa que además de ser acogedores seguramente por fronterizos

clima y tradiciones un paisaje natural y cultural digno de disfrutarse no puedo soslayar el empecinamiento del partido popular en no firmar con eh bildu como lo hace en juntas generales si hemos hecho un esfuerzo en pactar entre todos todos hemos cedido el empeño

sí me gustaría aprovechar para desmentir lo aquí afirmado por el pp sobre el modo de gestión que ha tenido el gobierno con este proyecto en el sentido en que al hablar de socializar la propuesta original del partido popular

la hemos propuesto los grupos enmendantes entre ellos el grupo nacionalistas vascos y respecto a nafarroa

nos consta que se está abriendo la posibilidad de que en el proyecto antes del dos mil quince se incorpore nafarroa y sí me gustaría entrometerme un poquito

no haya firmado pueda apoyar porque creo que un proyecto de este tipo merece la pena

el mensaje a los riojanos alaveses de que lo hemos aprobado por unanimidad para terminar

sino múltiples paisajes no es lo mismo verlo desde herrera o la población

no es lo mismo adentrarse en rioja en otoño que a principios de primavera

que recorrer el medioevo en labraza como no podía ser de otra manera quisiera terminar con una cita

que siempre me ha resultado sugerente para pensarla cuando se está ante algo tan espectacular como la rioja vista desde sierra cantabria

en el momento cuando nadie lo ve absolutamente nadie ver un paisaje tal cual es cuando no estoy en él y pienso yo

cuando yo allá estoy cuando no lo estoy viendo debe ser sobrecogedor muchas gracias

en primer lugar agradecer la aportación de los grupos que han enmendado y que han firmado la enmienda de transacción y a los grupos que van apoyar esta iniciativa en definitiva de lo que se trata es de apoyar

y para ello lo importante es la colaboración interinstitucional y señor tellería hasta este momento no se está dando usted lo sabe y tenemos la relación de respuesta

en todas las reuniones desde el inicio hasta el día de hoy por lo tanto lo que he dicho es que no se ha iniciado este procedimiento de la mejor

un dato yo reiterarme en el apoyo a esta candidatura y que tenga el mayor éxito posible

gracias presidenta esta iniciativa tiene dos objetivos fundamentales primer objetivo que este parlamento la congelación salarial incluida en los presupuestos generales del estado congelación salarial de los empleados públicos de los funcionarios es decir

no está de acuerdo con esa iniciativa aprobada por el gobierno de españa que diga que no compartimos esa medida injusta y ese nuevo recorte social obviamente no hay tiempo ni tampoco capacidad política

recorte impulsado por el gobierno de españa pero nos gustaría que al menos pueda salir de aquí una oposición contundente a esta medida absolutamente injusta y segundo objetivo que creo que

o incluso más que salga de este parlamento una declaración de apoyo al conjunto de los empleados públicos y de los funcionarios y de reconocimiento expreso al indispensable trabajo que realizan en una época en la que determinada corriente ideológica

no solo arrumbar con el estado del bienestar sino cuestionar además el trabajo que los empleados públicos y funcionarios realizan y cuestionar

su dedicación y su trabajo esta iniciativa de upyd

salvo que haya muchos parlamentarios que se equivoquen a la hora de votar da la sensación de que efectivamente la iniciativa original no va a salir adelante pero

nuestros dos objetivos que acabo de señalar por un lado que este parlamento diga que es injusta esa decisión tomada por el gobierno de españa y por otro lado

un segundo objetivo que creo que es tan importante como el primero que

reconozca expresamente la labor realizada por los empleados públicos y por los funcionarios ya digo que me atrevo a señalar que es casi más importante lo segundo que lo primero dado que como decía vivimos una época en la que hay representantes políticos e institucionales prestos a desprestigiar a los empleados

primero los desprestigian y luego congelan sus sueldos o recortan esos sueldos y después los siguen desprestigiando y cuestionando su labor y a continuación proponen nuevas reducciones salariales

durante los últimos años los recortes sociales en mayor o menor medida

del gobierno vasco gobiernos pésimos sin iniciativa y sin altura de miras y sin otro objetivo en muchos casos que defender a los suyos por eso en lugar de proponer determinadas medidas políticas en lugar de proponer determinadas reformas se apuntan al carro

aunque sean más injustas en este caso la congelación del sueldo de los funcionarios podemos recordar los últimos recortes sociales impulsados por el actual gobierno de españa recorte del sueldo de los funcionarios o congelación del sueldo de los funcionarios ampliación de la jornada de los funcionarios reducción de becas

drásticos recortes en educación repago farmacéutico

recortes a los pensionistas reformas laborales para laminar a los trabajadores reducción de derechos laborales recortes en dependencia

se amnistía a los defraudadores o mientras no se hace todo lo posible para luchar contra la o para luchar contra el fraude fiscal y todo esto mientras se descartan impulsar otras reformas indispensables que evitarían impulsar

que los diferentes gobiernos y por cierto no solamente el actual gobierno de españa tratan de presentar como absolutamente indispensables e inevitables es falso se pueden y se deberían impulsar otro tipo de medidas políticas y económicas para no recortar

y en este caso a los empleados públicos se podría y es lo que venimos pidiendo en los últimos tiempos con reiteración y sin éxito también

gastos superfluo e inmensas duplicidades e ineficiencias

esa reforma se podría llevar a cabo una reducción drástica de gastos superfluos y duplicidades de todo tipo se podría reducir la grasa

se podría reducir drásticamente el sector público societario para tratar de suprimir eliminar o reducir todas esas empresas y entes públicos que no sirven absolutamente para nada

a los amigos de unos o de otros se podría abogar

la supresión de las diputaciones provinciales con lo cual tendríamos un ahorro

de euros o se podría impulsar la necesaria fusión de municipios lo cual nos llevaría a un ahorro

millónes de euros anuales se podría impulsar reformas fiscales para tratar de tener un sistema tributario

más y mejor contra el fraude fiscal es decir se podrían hacer muchísimas cosas para no tener que aplicar recortes sociales

e indispensables y necesarias para hacer justicia y sacar al país de la situación en la que se encuentran medidas alternativas a los recortes

los intereses del partido político de turno esto es lo que básicamente se ha hecho también en euskadi y especialmente en el conjunto de españa no aplicar determinadas medidas para salvaguardar los intereses del partido político correspondiente

partidos políticos que anteponen sus intereses partidarios a los intereses de los ciudadanos no podemos olvidar por otro lado quienes son los funcionarios y los empleados públicos son los enfermeros o las enfermeras son los médicos

son los profesores son los trabajadores de la administración es decir aquellos que sostienen

y empeorar las condiciones de los empleados públicos implica empeorar los servicios públicos cuando se recorta el sueldo a los funcionarios cuando se congela

se recorta la prestación de los servicios públicos más necesarios esenciales en los últimos tiempos tanto el partido popular como el partido socialista han recurrido como digo a este fácil recurso en los últimos tiempos todos lo han hecho

como el partido socialista han impulsado o reducciones o congelaciones salariales y a nosotros ciertamente nos parece muy injusto y nos gustaría que al menos este parlamento diga que no está de acuerdo con esas actuaciones

por otro lado debemos cumplir la legalidad vigente y rechazamos también llamadas a la insumisión

de determinados particularismos que no nos llevan a ningún lado y que en nuestra opinión es otro de los dramas que está sufriendo el conjunto de los ciudadanos españoles y el país

particularismos que pretenden salvar al menos una parte del territorio de los recortes que impulsa el gobierno de españa esto únicamente nos llevaría una mayor desigualdad pensamos que el objetivo debería ser cambiar las políticas económicas del gobierno cambiar en definitiva el gobierno cambiar esas políticas formamos parte de españa y de europa y obviamente sus decisiones nos afectan y las del gobierno central llevan tiempo

no porque vengan de españa sino porque vienen de un gobierno determinado que toma determinadas medidas claramente injustas y contraproducentes

también del gobierno de españa se han impulsado otra serie de recortes por lo tanto el problema no es como algunos plantean o quieren plantear el problema no es españa

en lugar de otras y nosotros hacemos oposición al gobierno en el congreso de los diputados y hacemos oposición al gobierno también en este parlamento pero ya digo que no vamos a pedir que se incumpla la normativa obligatoria por lo tanto nos encontramos ante una medida que perjudicará a un sector de la sociedad ya suficientemente castigado por la crisis y por los recortes y a la propia prestación de los servicios públicos

traer esta iniciativa que tiene esos dos objetivos rechazar la congelación salarial incluida en los presupuestos generales del estado la congelación salarial de los empleado públicos y por otra parte que este parlamento expresamente que los funcionarios y que los empleados públicos hacen una labor fundamental y que estamos en contra de aquellos partidos políticos o instituciones
o representantes políticos que tratan de cuestionar y desprestigiar a estas personas nada más y gracias eskerrik asko

socialista rechazamos de plano la congelación salarial de los empleados públicos porque para nosotros lo que esto supone es prorrogar y ahondar más en los recortes de los últimos años e incidir además en un recorte sobre un colectivo

un castigo durante muchos años demasiado tiempo pagando los platos rotos de otros el porcentaje de pérdida de poder adquisitivo de algunos sectores de la administración pública

del daño a los trabajadores puesto que se está iniciando un camino de difícil retorno de desmantelamiento de los servicios públicos esenciales con la consiguiente pérdida

porque no podemos obviar como ya citaba el señor maneiro también que el grueso de los servicios públicos son sus empleados públicos y que muchos servicios públicos al final lo son con sus caras y sus ojos y estamos pensando en educación que son veinticuatro mil profesores y profesoras

o en el personal sanitario que rondan los treinta mil en esta comunidad autónoma así pues son estas las personas contribuyendo a mantener la calidad en los servicios públicos es hasta cierto punto comprensible que los gobiernos al comienzo de la crisis

de los ingresos públicos sin capacidad de maniobra por razones de tiempo para hacer las correcciones necesarias para ir acomodando los gastos corrientes a la realidad cumplieran así con las exigencias marcadas por bruselas y acudieran a reducir el capítulo primero y después a contenerlo pero esto que podían encontrar una justificación

deja de ser comprensible transcurridos ya casi cinco años desde el inicio de las medidas de contención del gasto de personal es por eso que le exigimos al gobierno de españa que ya va siendo hora de que la contención del gasto público se realizara en otras partidas que no sean las de personal

excelentes debieran haber comenzado a tener un efecto directo en las cuentas públicas y está claro que esto no se aprecia y que la inercia natural lleva al gobierno nuevamente a hacer recaer el grueso de los esfuerzos económicos en los trabajadores públicos

de doble filo porque por un lado perjudica y empobrece a los trabajadores públicos y por otro traslada a la opinión pública

pero no por ello menos peligrosa de que los responsables del gasto público en su mayor medida son los funcionarios que son una casta privilegiada y que además como desliza algún responsable público últimamente que su productividad

nuestro sistema de bienestar construido con tanto esfuerzo y es que hay un mito que para algunos grupos políticos alimentan además sin cesar

es disparatada los representantes públicos yo creo que debemos de ser muy serios a la hora de tratar estos asuntos y desde luego utilizar las estadísticas y los números y debemos mirar las estadísticas europeas la ratio española de funcionarios públicos de empleados en el sector público por ser

está por debajo de países como francia e italia y si nos venimos a euskadi podemos decir que la ratio es de la parte media baja de la tabla con respecto

por tanto instamos al gobierno de españa a que corrija esta incidencia negativa que la congelación va a suponer en los trabajadores públicos asimismo también

de las que nos dota nuestro autogobierno para paliar el efecto que estas medidas pudieran tener en los trabajadores de la administración pública vasca porque aunque desde

aunque a ellos les gusta mucho utilizar ese latiguillo y debo decir

no solo a esta cuestión sino a tantas otras por lo tanto es por lo que pedimos al gobierno vasco que

desde sus competencias medidas paliativas de esta cuestión porque a nadie

en varias ocasiones aunque hay algún grupo en esta cámara que no ha querido

que el gobierno de españa tiene competencia en el salario base pero no en otras cuestiones salariales y por lo tanto bien el estado

pero la comunidad autónoma tiene competencia exclusiva para otro tipo de complementos salariales que pudiera poner en marcha para compensar la congelación por lo tanto nosotros desde el grupo socialista lo que

general negociando con los sindicatos y tratando de alcanzar un acuerdo que palie estas medidas tan negativas y debo decirle señor maneiro que

pero debería de reconocer usted que sale mejorada porque incorpora no solo la proposición original sino que además establece mecanismos para conseguir lo que usted persigue aunque usted no lo haya suscrito

este tipo de medidas se viene adoptando por el gobierno estatal unilateralmente imponiendo su aplicación en nuestra comunidad autónoma desde hace mucho tiempo no me voy a remontar

o la época de gobierno de josé maría aznar pero más recientemente en la época ya de gobierno de rodríguez zapatero en el año dos mil diez

el déficit iba a tener que adoptar una serie de medidas para ahorrar en el gasto público entre ellas ya aplicó la reducción del sueldo de los funcionarios en el año dos mil diez en un cinco por ciento de media y aplicó también la congelación salarial

posteriormente cuando en noviembre de dos mil once es nombrado como

este partido que había sido totalmente contrario y critico con las medidas

nada más llegar adopta la decisión de eliminar la paga extra para el año dos mil doce

también congeló salarios para el dos mil trece y ahora en dos mil catorce anuncia

de seguir con esas mismas medidas pero todas estas medidas

las han adoptado de forma unilateral se han adoptado de forma unilateral sin ningún tipo negociación ni con los agentes sociales

de nuestra comunidad autónoma todo ello con carácter de legislación básica y

amparándose siempre en los graves desequilibrios de la economía española en el control del déficit público del gasto público

ez dituztela zorpetze maila edo defizit edo finantzaketa egoera berdinak izan es decir aplicando tabla rasa a todos sin importar

akordioak erdiesteko lan baldintzen inguruan porque en definitiva todas estas decisiones impuestas afectan directamente a nuestro autogobierno

nos obligan adoptar medidas que perjudican a las personas que vivimos en la comunidad autónoma de euskadi y en este caso concreto

la implementación de estas medidas en los últimos años ha supuesto que las personas que trabajamos en la administraciones públicas vasca habremos perdido entre un veinte y un treinta por ciento de capacidad adquisitiva por lo tanto

limitan nuestras competencias y perjudican gravemente los intereses de nuestros empleados públicos

en la comunidad autónoma de euskadi eta ibarretxe lehendakariak ere

en el fondo pretenden lograr un estado uniforme pretenden uniformizar el estado centralizarlo sin tener en cuenta la especificidad y la personalidad diferenciada de nuestra comunidad autónoma no se aceptan nuestros rasgos distintivos

particularidades que están recogidas en el estatuto no se acepta que

para nuestra realidad se busca desdibujar nuestro autogobierno

si mediante legislación básica se recortan de forma unilateral el ejercicio de competencias que nos corresponden posteriormente se judicializa el ejercicio del autogobierno a través de sentencias del tribunal constitucional

con las condiciones laborales de los empleados públicos y finalmente esto tiene consecuencias perjudiciales para nuestros empleados públicos y para nuestros ciudadanos

todavía existen muchas transferencias pendientes se está desarrollando una política de ataque y recorte del autogobierno por eso es necesario abordar la actualización y la adaptación del estatuto y del autogobierno para adecuarlo a las demandas reales de la sociedad vasca desde luego mucho más interesa en adaptarlo

que en celebrar o no celebrar su festividad eta lan hori

de que aquí hay algo que no funciona que distorsiona nuestro autogobierno de que es necesario

bien tal y como se ha dicho aquí volvemos a debatir en esta cámara el asunto de las retribuciones de los funcionarios públicos y en primer lugar y también dado lo que se ha dicho aquí este grupo parlamentario se ve en la obligación de realizar

un sincero reconocimiento al ingente esfuerzo y a las grandes dosis de sacrificio que está realizando

y de manera muy especial el cuerpo de los funcionarios públicos es cierto y es de justicia reconocer que los funcionarios están sufriendo en primera persona los efectos de la crisis y que por tanto como decía merecen un reconocimiento específico ya que gracias a su esfuerzo

las soluciones de mañana por tanto las medidas adoptadas como la que hoy se somete a debate y votación siendo conscientes de que son impopulares y dolorosas para el propio gobierno de españa se consideran imprescindibles si queremos

presupuestaria como paso previo para salir de la crisis e iniciar la tan ansiada recuperación económica por lo tanto

no podemos analizarla de forma aislada y a extraerla de la coyuntura que nos ha tocado vivir ni del contexto político del que formamos parte como se ha dicho aquí creo que

y desde luego nosotros también creemos que hay que dejarlas claras desde la unión europea y como consecuencia de la pertenencia a la misma se derivan una serie de compromisos que son la seriedad y el respeto a los compromisos adquiridos afortunadamente

y la credibilidad internacional perdida durante el mandato de los precursores de la ceja afortunadamente como decía como no somos una república bananera tendremos que cumplir con nuestros socios comunitarios

está tocando vivir esos primeros años de la crisis que ya duran bastante verdad señora mendía debemos tener en cuenta de dónde venimos y por qué venimos venimos de un escenario económico que acumulaba un déficit cuando lo coge el gobierno del partido popular un déficit presupuestario de nada más y nada menos que noventa mil millónes de euros

por lo menos a una se le escapa para hacernos una idea aproximada es el equivalente a casi diez veces el presupuesto total del gobierno vasco

por lo tanto no estamos hablando de simple calderilla sino que hablamos de cifras

a punto de llevar de forma literal a la bancarrota económica a nuestro país y es cierto yo puedo estar de acuerdo señor maneiro con algunas de las medidas que usted propone pero que ya está llevando a cabo el gobierno del partido popular

administración pública o como es la reducción de los costes y los gastos corrientes y entendemos

desde el respeto que le tengo a usted y a su grupo que como partido minoritario en el conjunto de españa y como partido aún más minoritario en el espectro político vasco usted puede permitirse determinadas licencias y realizar ciertos discursos cargados de populismo y demagogia

pero quienes han sido elegidos para dirigir

tenemos que realizar análisis serios prudentes y rigurosos algunos se pueden permitir el lujo y no lo digo únicamente por usted señor maneiro

es sabia y es perfectamente consciente de que este país no está todavía para regalos ni siquiera de oídos quizás en un futuro que yo confío que sea cercano y realizando una buena gestión política

y que le pertenece por derecho propio que no es otra cosa que recuperar la situación económica y el proyecto vital que tenían con anterioridad a la llegada de la crisis incluidos por supuesto los funcionarios pero para ello la estabilidad presupuestaria debe ser la base para impulsar el crecimiento y la creación de empleo en la economía para garantizar el bienestar de los ciudadanos hay que crear un marco adecuado de oportunidades a los emprendedores y ofrecer una perspectiva de futuro más próspera justa y solidaria y salvaguardar la estabilidad presupuestaria

es un instrumento indispensable para lograr estos objetivos

que son los pilares sobre los que debe descansar nuestro estado de bienestar

pero que fue negado por activa y por pasiva hasta llamar antipatriotas

esto agotó de forma muy rápida los márgenes de maniobra de la política fiscal y presupuestaria

una política de ajuste que permita recuperar la senda del equilibrio en nuestras cuentas públicas y es esta la labor que está llevando a cabo el gobierno encabezado

ejes fundamentales la reducción del déficit público y las reformas estructurales porque son la confluencia de ambas las que están permitiendo aunque todavía muy de lejos

del túnel la garantía de estabilidad presupuestaria es una de las claves de política económica que está contribuyendo a reforzar nuestra economía está contribuyendo a dar más

y más confianza y buena muestra de ello que infundimos a los inversores una mayor confianza es que la prima de riesgo está descendiendo y esto no es un dato que dicho así sea baladí sino que supone una rebaja de ocho mil millónes de euros para el ejercicio dos mil catorce

al presupuesto que maneja el gobierno vasco pues bien nuestra filosofía de gobierno es la austeridad pero no parece que sea solamente la filosofía

austeridad garantía y crecimiento lo primero ordenar las cuentas y compromiso de estabilidad presupuestaria con las finanzas públicas página diez del programa del partido nacionalista vasco vigor presupuestario y austeridad para sacar a euskadi de la crisis iñigo urkullu en la campaña electoral del dos mil doce en un contexto

con las políticas de consolidación fiscal y reducción del gasto

y existen también otras citas los funcionarios desde la seguridad de su puesto de trabajo deben ser solidarios con el resto de trabajadores serán recortes acordados que necesariamente deben hacerse en el ámbito público porque en el privado se están cerrando empresas y muchas personas

desde la función pública también se impone una reflexión de solidaridad no solo intergeneracional entre personas sino también entre el sector público y privado no se puede vivir con este tren de vida y en la función pública con la seguridad del puesto de trabajo como está la sociedad y como está nuestro alrededor

sino el señor egibar en noviembre del dos mil doce

el gobierno tiene dos preocupaciones principales el paro y el déficit público es imprescindible y urgente realizar un nuevo esfuerzo extraordinario de ajuste y austeridad presupuestaria

el déficit público el esfuerzo de reducir el salario de los empleados públicos es para que otros muchos ciudadanos puedan seguir protegidos ante la situación de desempleo que padece es necesario que nos impongamos todos exigencias adicionales de austeridad y rigor y que reforcemos la confianza de nuestra economía tan importante son las medidas de austeridad como las reformas estructurales y las medidas propuestas son dolorosas pero inevitables pensarán ustedes que esto lo ha dicho mariano rajoy en sede parlamentaria pues no señorías

maría teresa fernández de la vega en mayo de dos mil diez ahora nos acabamos de enterar que claro

y no había margen de maniobra pero claro es que esos primeros años de la crisis en algunos sitios de españa

porque el partido socialista ese partido del no a los recortes

de los salarios de los empleados públicos no se debe haber enterado de ello en andalucía por lo tanto recomendamos señora mendia que estas afirmaciones que usted ha hecho hoy aquí

se las traslade y lo décimos porque la junta de andalucía ha anunciado que para el año que viene mantiene la eliminación de los complementos autonómicos de las pagas extras de navidad y julio

no sé si el señor portavoz del partido nacionalista vasco lo que se refiere es eso que de lo que se trata es de que se puedan hacer los recortes pero desde el autogobierno es decir que los funcionarios andaluces señora mendia alrededor

los complementos autonómicos de las pagas extras y esto por citar algunos ejemplos va a suponer que una enfermera va a tener una merma anual de cuatro mil euros

claro que como lo hacen ustedes seguramente le llamarán de otra forma no serán recortes serán ajustes eso sí y desde luego

o según unas medidas las adopten ustedes o las adopten otros

de mirar como le digo andalucía donde los recortes en sanidad y en educación son más que patentes

que la gestión política ya sea desde el gobierno o desde la oposición debe ejercerse con seriedad y responsabilidad y que entendemos que desde la oposición existe un margen para la demagogia pero creemos que en política no todo vale no todo vale sin caer en injustificados triunfalismos tenemos que reconocer que comenzamos

y ello ha sido gracias al esfuerzo colectivo de millónes de españoles que han sabido entender que las medidas impulsadas aunque dolorosas eran imprescindibles y quiero reiterar una vez más ha sido gracias también al esfuerzo
de los funcionarios cuyo trabajo desde aquí quiero volver a reconocer nada más muchas gracias eskerrik asko llanos anderea eh bildu taldearen ordezkaria den arrondo andereak dauka hitza

es una de las razones por las que no hemos presentado enmienda nuevamente se propone rechazar lo que hacen otros en madrid sin asumir ni exigir ningún compromiso al gobierno vasco

es el momento de cambiar de rumbo y acabar con las políticas de recortes las de madrid y las de aquí se dice

intervenciones reconocimiento y apoyo a los trabajadores y a las trabajadoras empleados públicos nuevamente palabras

es mantener y mejorar sus condiciones laborales lo que han ido perdiendo y siguen perdiendo durante los últimos años y defender e impulsar sin ninguna duda también en los presupuestos los servicios públicos cosa que se sigue sin hacer guk uste dugu

izan behar da izan behar dugu aurrera egiteko el veintinueve de octubre en un medio de comunicación se daba a conocer

el sueldo de sus funcionarios no es que la política de recortes desarrollada por dicho gobierno

pero parece que cuando se quiere sí se puede tomar decisiones como subir el salario de los trabajadores y trabajadoras del sector público ayer conocimos también que la diputación de gipuzkoa mantendrá

ya lo hizo con la paga extraordinaria de diciembre del dos mil doce

maneiro jauna gracias presidenta se puede decir que no ha habido

nos conocemos todos y conocemos las argumentaciones

iniciativa ya sabíamos perfectamente que nos íbamos a encontrar

particularismos que iban a reclamar la no aplicación de una serie de medidas que son de obligado

de los grupos parlamentarios iba a lanzar sus soflamas en algún caso sus argumentos para defender

insolidario o el sálvese quien pueda o la independencia

lo que nos sacaría a todos de la situación de crisis y nos llevaría a una situación mejor

todos estos argumentos y por eso digo que no ha habido grandes sorpresas la señora llanos

populismo nos acusaba de populismo por proponer permanentemente por cierto tanto aquí como en el congreso de los diputados medidas alternativas a los recortes sociales impulsados por los diferentes gobiernos y por criticar

el tema es que nosotros no solamente criticamos los recortes sociales sino que presentamos continuamente también aquí y en el congreso de los diputados una serie de medidas que ni este gobierno ni el gobierno de españa quiere aplicar por una sencilla razón

antepone sus intereses particulares sus intereses de partido político a los intereses de los ciudadanos

todos los gobiernos en los últimos tiempos y también el gobierno vasco por cierto señora llanos por aclarar y por si

votáramos por puntos yo creo que no se trata de reconocer el sufrimiento

no se trata de reconocer lo mucho que han sufrido los funcionarios como consecuencia de los recortes que ustedes han impulsado no se trata de reconocer ese sufrimiento sino de decir que realizan un trabajo que es absolutamente esencial hay que impulsar nuevos recortes contra los funcionarios y que no estamos de acuerdo con los recortes que se han impulsado contra los funcionarios por distinguir

por puntos esa transaccional no se trata de reconocer lo mucho que han sufrido sino se trata de reconocer

ante la pretensión de algunos partidos políticos de algunos representantes políticos de algunos representantes institucionales de tratar de desprestigiar el trabajo que estos ciudadanos realizan efectivamente

público del rigor y de la austeridad lo mismo que hacen todos los gobiernos cuando impulsan recortes sociales lo que han hecho todo ello

habremos salido de la crisis o nos dirán que hemos salido de la crisis y tendremos una ciudadanía arruinada una ciudadanía empobrecida

laminado dejen ustedes por favor de tomar medidas para salir de la crisis

están saliendo ahogados y están saliendo muy perjudicados la mayoría de la sociedad precisamente la parte más débil de la sociedad en muchísimos casos por lo tanto

porque estamos cada día peor estamos cada día peor las medidas gracias a las medidas que ustedes están aplicando medidas claramente injustas y contraproducentes la señora mendia ha venido en su intervención a justificar el recorte del sueldo de los funcionarios que aprobó el gobierno de zapatero porque efectivamente aquel si que parecía que era

del país que los partidos políticos critican las medidas que aplican los gobiernos cuando están en la oposición pero aplican las mismas medidas cuando están en el gobierno cuando salen del gobierno después de aplicar determinadas medidas critican esas mismas medidas que aplica el nuevo gobierno y es lo que ha hecho

los recortes sociales son necesarios cuando el partido político correspondiente cuando mi partido político los impulsa cuando los impulsa el otro partido político son criticables podemos recordar que ya el señor felipe gonzáles congeló el sueldo de los funcionarios en mil novecientos noventa y cuatro aznar hizo lo mismo

bajó el cinco por ciento el sueldo de los funcionarios en el dos mil diez

hubo congelación el nuevo gobierno rajoy primero congelación y después supresión de la paga extra dos mil trece nueva congelación etcétera

anteponen los intereses partidarios antes de los intereses de los ciudadanos y yo en relación a la enmienda transaccional sí que votaría

dos objetivos por un lado criticar los recortes impulsados por parte del gobierno de españa que irremediablemente nos afectan porque son de obligado cumplimiento y por otro lado decir claramente desde este parlamento que no estamos dispuestos a que

de la forma en que algunos partidos políticos están haciendo en los últimos tiempos a los empleados públicos por lo tanto votaríamos estaríamos dispuestos a votar a favor del primer punto

del segundo de los puntos es decir estaríamos dispuestos a votar que este parlamento rechaza las medidas unilaterales impuestas por el gobierno de españa
maneiro amaitzen joan mesedez no por ser medidas digamos unilaterales o impuestas sino porque son injustas

son medidas de obligado cumplimiento y nosotros no podemos hacer otra cosa que criticar esas medidas a pesar de que tengamos que cumplirlas

es cambiar las medidas políticas las medidas económicas que se están impulsando también por parte

ni la independencia ni el sálvese quien pueda es cambiar al gobierno

cambiar las medidas que está aplicando este gobierno nada más y gracias eskerrik asko maneiro jauna

el drama señor maneiro es que a la vista de la lectura que ha hecho usted de la transaccional ha traído una iniciativa a este parlamento simplemente para decir que los funcionarios son unos magníficos trabajadores cosa que todos los de esta cámara compartimos que son los que mantienen los servicios públicos hacer una declaración una mera declaración de rechazo a la congelación que aparece en los presupuestos generales del estado hombre yo creo que se puede hacer algo más porque habla usted de dramas y yo creo que ya empieza a ser un drama también los discursos demagógicos con los que ustedes sí y otra también nos vienen a esta cámara y nos reproducen incluso a veces debates que no tienen mucho sentido tampoco en euskadi lo que se ha tratado aquí de hacer es de instar no solo al gobierno de españa decirle que rechazamos su congelación sino de utilizar las herramientas del autogobierno vasco para compensar a los funcionarios es decir utilicemos el autogobierno para impedir

compensarla la verdad es que señora llanos

desea ir allí desde luego yo prefiero al de la ceja que al del bigote y creo que en su partido también

a la crisis económica que su mera presencia en el gobierno de españa iba a ser ya la solución maravillosa y desde luego se está viendo en datos que claramente no está siendo así

a tres puntos por encima de la que se encontraron ustedes cuando llegaron al gobierno

en españa y siguen ustedes además desmantelando por un lado el estado social que con tanto esfuerzo hemos construido durante tantos años y por otro lado desmantelando como aquí también se ha dicho el estado autonómico en el que desde luego los socialistas creemos vamos a asistir a un escenario en dos mil catorce de seis millónes de parados

está ayudando a muchas familias que tienen muchos miembros en paro que han ido a la casa de sus padres a vivir a mantenerse

he entendido que se recorte y que se congele en unos momentos de urgencia incluso en un año de gracia de ustedes de primer año de legislatura pero hombre

de mejorar el funcionamiento del estado podría haber sido hora ya de que ustedes

porque me habla usted de que se recupera españa quién se recupera

los pensionistas que son más pobres que haya menos trabajadores

los enfermos crónicos con el copago ese es el escenario de mejora de españa y creo señora llanos entiéndame que esto no debería de ser el debate de hoy el debate de hoy

al ámbito vasco es decir estamos en el parlamento vasco qué podemos hacer nosotros por nuestros funcionarios y ahí es donde

parece ser que quería intervenir en el primer punto del orden del día de hoy y no le han dejado y bueno le ha tocado en este y ha metido usted la cuña de la fiesta de euskadi

hubiera traído alguna iniciativa legislativa más productiva para el país mejor para los ciudadanos vascos porque creo que el tener la fiesta de euskadi o no tenerla no creo que vaya a contribuir en demasiado a disminuir el desempleo en este país a mejorar las circunstancias económicas de nuestros empresarios y por lo tanto lo que se espera de su gobierno es que traiga iniciativas legislativas a esta cámara porque no fue capaz ni siquiera de aprobar sus primeros presupuestos

pero en el primer año aprobó tres leyes ustedes ninguna

eskerrik asko presidente andrea bueno señora llanos no es cuestión de ser impopulares

yo se lo reconozco en caso de que haya que tomar ese tipo de medidas

ha acertado a la primera a lo que me estaba refiriendo pero no nos vendan la moto

pierde credibilidad cuando se escuda en la herencia de la situación económica

madrid qué ocurre en esas comunidades autónomas nosotros queremos que explique

por qué si aquí cumplíamos con todos eso criterios macroeconómicos que establece europa

nos deben imponer las mismas condiciones que al resto de comunidades que no las cumplían así de simple no busque excusas madrid psoe andalucía no no

pero si ya las cumplíamos precisamente por eso están en el programa porque es una cosa que siempre por responsabilidad hemos cumplido no hace falta que venga nadie

el tema de la fiesta hablamos aquí anteriormente debe ser

del debate lo que nos une debe ser la fiesta no es el estatuto al parecer no es el contenido del estatuto no es que haya que respetar el contenido

ezagutzen ditugu kasuak eta hau ez da no es un caso de amigo imaginario y tal que me han dicho en una cafetería sino que es un caso real hay gente que trabajaba en el ayuntamiento de donostia temporalmente

a la extra un ejemplo claro gero

señora presidenta por empezar por una frase que se ha dicho aquí que es muy

comparen cómo dejó españa el del bigote y cómo lo dejó el de la ceja solamente eso y hay que poner

sobre blanco algunas de las cosas que se han dicho aquí o mejor decirlas aquí

el acta de la sesión plenaria porque uno tiene que escuchar cosas

en situación urgente según usted señora mendia y no hay margen de maniobra me quiere explicar qué margen de maniobra ha tenido el señor rajoy con noventa mil millónes de déficit

eso no es urgente y usted cree que eso se soluciona en seis meses

de ustedes me creo que piensen que se soluciona en seis meses porque señor maneiro

qué sería política partidista y qué sería populismo

nada hacer una política de brazos caídos tomar medidas que gusten a la gente pero que al final los hubieran llevado a que españa estuviese intervenida eso es hacer populismo

a ningún gobierno le gusta hacer recortes a ningún gobierno le gusta bajar los salarios a los funcionarios

porque eso no da popularidad sino lo contrario señor maneiro pero es que ser responsable y no ser partidista significa tomar decisiones aunque no gusten y aunque a uno precisamente no le hagan la ola por ello porque ya le digo señora mendia la paga se va a devolver está prevista

por qué no se quejaron en ese momento por qué no arbitraron políticas de autogobierno para pagar a los funcionarios si aquí estábamos tan bien si la comunidad autónoma de euskadi estaba tan bien

por qué no hicieron nada en eso acatando vamos de pe a pa bajar el medio punto pero es que ya le estoy diciendo

lo dicen sindicatos de trabajadores que ustedes les acusan a ellos a los funcionarios sindicatos de funcionarios de la mala situación que tiene

y esos mismos funcionarios son los que hablan de su eufemismo de ese eufemismo de que cuando los gobiernan los socialistas no se privatiza se externaliza

y esto no lo dice el partido popular eso lo dicen los sindicatos

defienden y esos recortes que ustedes critican en otros sitios le voy a decir en andalucía la sanidad esa que ustedes dicen que nosotros hemos

camas en los pasillos gente esperando cuarenta y ocho horas en un sillón

por horas de guardia menos que el mir en otras comunidades y una deuda acumulada de dos mil ochocientos millónes

eso es la forma de gestionar de andalucía y ya le digo han reducido los complementos salariales por segundo año consecutivo

ese autogobierno que les permitiría hacer más cosas que al resto precisamente utilizan el autogobierno para colocar a los funcionarios en mucha peor situación que los del resto

si ustedes aquí los altos cargos cobraron la paga extra prometieron devolverlo y todavía se está esperando que lo devuelvan todavía se está esperando a que devuelvan la paga extra que esos ciento setenta y ocho altos cargos cobraron y

si yo se lo he dicho si el ejemplo de los funcionarios públicos que se deben sacrificar lo han puesto ustedes si lo han puesto

qué me quiere decir bueno y no me pongan a cataluña y gestión nacionalista porque vamos ahora van a subir pero es que llevan un treinta por ciento acumulado de poder adquisitivo perdido o sea que vamos y sus amigos los amigos de esta bancada diciendo que sí

hay que recortar pero desde el autogobierno pero que lo recortemos con la boina puesta

y no nos olvidemos que una cosa hay que dejarla clara están hablando ustedes de recortes se va a congelar el sueldo y la inflación prevista para el año que viene es cero coma uno por ciento

aquellos señores y que aquí se acató sin decir ni pío pero

ustedes les voy a decir una cosa como en tantas otras cosas

y ustedes recogen las nueces y están encantados de que ese ahorro que van a obtener ustedes en los presupuestos